si gracias presidenta buenos días señorías efectivamente señor maneiro parece que hoy vamos ha hacer ese debate que el gobierno no quiso hacer hace dos meses cuando

las circunstancias han cambiado señorías sí y aunque se intentó soslayar y tapar ese fracaso propio con acusaciones ajenas sobre supuestos intereses electorales

efectivamente y aquellas posiciones reflejadas en enmiendas a la totalidad eran absolutamente

ya lo dijo el consejero en una respuesta a la interpelación de la que deviene esta moción y en una pregunta posterior de mi propio grupo el gobierno

en la línea en la que hemos venido proponiendo la mayoría de esta cámara el gobierno rectifica señorías bien pero no puede dejar pasar más tiempo

tan fácil un ejecutivo hacer una ley porque sabe de antemano la posición de los grupos que están reflejadas en las seiscientos veinticinco enmiendas

en su día y que están a disposición pública desde el pasado veintitrés de marzo así que ha cambiado el contexto y parece que ha cambiado la actitud del gobierno pero señorías no ha cambiado la posición del grupo socialista

a hacer una defensa integral del sector público vasco y de la transparencia radical como principio básico de funcionamiento para el futuro es por tanto un debate en positivo un debate que analiza cómo debe organizarse nuestro sector público para ser más eficaz en la prestación de servicios y cómo de transparente queremos que sea ese funcionamiento por eso pedíamos la devolución del texto propuesto por el gobierno

nosotros consideramos fundamentales como saben ya en la pasada legislatura se habían dado determinados pasos pasos que sin necesidad de cambios legislativos mejoraban tanto el sector público como

y se empezaron a diseñar esas disposiciones que transformaban esas medidas parciales en una reflexión de fondo fruto de aquella reflexión se anunció

y una ley de transparencia que como saben ninguna tuvo el recorrido legislativo en aquella legislatura ni tuvo la oportunidad de llegar a esta cámara no obstante

en esta legislatura así lo recogimos en nuestro programa electoral y trajimos de hecho la ley de incompatibilidades que como todos ustedes recuerdan espero acabó aprobándose por unanimidad

en el caso de la transparencia señorías el gobierno dijo querer regularla dentro de otra ley más amplia a la que nos estamos refiriendo hoy y nosotros consideramos que

esa iniciativa a quien tiene la responsabilidad de gobernar

la verdad es que el resultado fue un fiasco porque se nos remitió una ley caduca falta de ambición e inservible en la mayoría de su articulado era una ley llena de renuncias renunciaba a utilizar todo el autogobierno para ordenar esa materia y dejaba que fuera la ley estatal el eje

duplicidades y simplificar el entramado en el que ahora se pierden los ciudadanos al relacionarse con las distintas administraciones y renunciaba

dejando escapar a gran parte del presupuesto público de ese control que le es exigible del control sobre cómo se gasta

heredó el mayor avance de transparencia que se ha producido en euskadi el gobierno del lehendakari

el perfil del contratante la regulación de la administración electrónica una experiencia de apertura acreditada y reconocida internacionalmente

y frente a ese avance incontestable que recibió de su predecesor cuando le toca dar forma legal a ese compromiso este gobierno pretendía dejarnos en este caso sin una herencia que mejor a beneficio de inventario

una mala copia de la timorata y absolutamente insuficiente legislación estatal

cabeza a la cola en materia de transparencia echábamos en falta por ejemplo algo tan elemental al que también se ha referido el señor maneiro como un capítulo dedicado al régimen sancionador en caso de incumplimiento echábamos en falta vocación política de ordenar

y en cuanto al sector público echábamos en falta la intención de poner orden en todo el sector público también en los entes forales y locales para los cuales ni siquiera se establecían principios generales que dieran coherencia al entramado público vasco

supone asumir la situación actual de reparto competencial y su articulación territorial del país y esto cuando el propio gobierno ya ha remitido al parlamento

no tiene sentido ni tenía sentido que se aborde una regulación legal

y además ignora otras iniciativas parlamentarias

en cuenta el compromiso de este gobierno de

los socialistas señorías queremos que se definan con precisión todos

el funcionamiento de lo público organismos autónomos entes públicos de derecho privado sociedades públicas fundaciones consorcios

se regule bien esimprescindible también en la ley el régimen de personal y un control exhaustivo del presupuesto de todo ese sector público con objetivos de eficiencia de control y evaluación del cumplimiento de los fines para los que fueron creados esos entes y exactamente igual es imprescindible un objetivo claro

entramado que es complejo y en demasiadas ocasiones ineficaz y excesivamente

con contundencia a la propuesta del gobierno porque los ciudadanos que es en definitiva a quienes representamos nos exigen más a las administraciones públicas la sociedad vasca exige una administración moderna adecuada a las necesidades actuales que aporte valor

que se pueda seguir el rastro de cada euro público el gobierno no quiso que pudiéramos confrontar estas posiciones en el debate

que para entonces y para ahora sirve afirmar que nosotros consideramos

que el gobierno debe remitir un proyecto claro ambicioso con vocación de apostar por la ordenación y simplificación del entramado institucional vasco por la evaluación de políticas públicas por la administración electrónica por la transparencia radical que obligue a las administraciones públicas a estar al día

de la ciudadanía porque la incapacidad de un gobierno no puede demorar más el cumplimiento de una exigencia de ese tipo ya lo dijimos

más y que nos iba a dejar al socaire como digo de la absolutamente insuficiente

del gobierno de españa ahora el gobierno sin embargo el gobierno vasco se ha comprometido a hacerlo y en este debate de hoy lo que queremos defender es que lo haga con el tiento que le faltó al anterior

una mayoría de esta cámara dos leyes separadas ambición sin complejos por actuar en todos los niveles institucionales que atiendan la demanda ciudadana de eficiencia en la prestación de servicios y transparencia en la utilización de recursos y que se haga desde el más amplio consenso porque señorías estas dos leyes están llamadas a perdurar a lo largo del tiempo

jamás tuvo tan fácil un gobierno hacer leyes y hacerlo con rapidez ahora la responsabilidad es suya para que esto sea posible y esto en definitiva señorías es lo que recoge nuestra enmienda la enmienda de transacción que hemos firmado

el gobierno efectivamente siguiendo las indicaciones expresadas en esas enmiendas no en las de totalidad sino en las parciales de la cámara está reelaborando barkatu el texto

de que tuviéramos el debate de las enmiendas a la totalidad en este parlamento decidió que aquel debate no debía darse en este hemiciclo escudándose

y electoralismo a los grupos que presentábamos aquellas enmiendas y lamentablemente esas acusaciones las mantuvo hace quince días aquí

y por lo dicho en esta última interpelación pareciera que el gobierno se ha creído su propio argumentario y por lo tanto ni siquiera ha entrado a analizar el contenido

no entenderíamos de ninguna de las maneras que se perdiera la oportunidad de articular un sector público vasco unificado y a su vez una administración de más eficiente

desde euskal herria bildu como muchos de los agentes económicos y sociales que se han pronunciado al respecto consideramos imprescindible que dispongamos de una ley que facilite el correcto manejo de los recursos públicos y ahonde de la administración una ley que dote al conjunto del sector público vasco de unos objetivos fines y principios comunes en el compromiso con la transparencia el acceso a la información el buen gobierno

unas leyes en definitiva que permitan a la administración responder de manera adecuada a las demandas de la ciudadanía y se conviertan en un agente vertebrador

como ya se ha dicho hemos firmado una transaccional con los grupos del pnv y del partido socialista de euskadi transaccional que demuestra que nuestra postura ante el proyecto fallido de la ley de la administración pública del gobierno del señor urkullu era una postura firme y constructiva

que viene a fijar el marco de aplicación de las dos leyes el sector público vasco en su conjunto tanto común como foral y local transaccional

e interpretaciones malintencionadas del señor erkoreka que repitió

corregidos el grupo del pnv ha cambiado su postura respecto al ámbito de aplicación por lo que esperamos que también lo haga el gobierno vasco benetan

no éramos partidarios de separar la ley de administración pública vasca en dos proyectos de ley el regular por un lado lo relativo a transparencia y el buen gobierno y de forma separada

no éramos partidarios de reproducir en euskadi el esquema legislativo español que separa los dos ámbitos

que establece las bases de su estructura y su funcionamiento realmente no acabamos de entender por qué es mejor una regulación que separa la organización y el funcionamiento de la transparencia no entendemos pero como he dicho anteriormente entendemos o que no es un debate de fondo

y asumimos nuestra posición minoritaria en este sentido y no vamos a obcecarnos en debates estériles bestalde

pública de la participación no compartimos con que el proyecto de ley fuera una copia de la ley estatal que le faltara ambición y que no desarrollara el autogobierno todo lo posible como se ha dicho

es cierto que parte de la normativa básica del estado pero también añadía más elementos

y adaptaba en muchas ocasiones las reglas generales a las peculiaridades de la organización autónoma vasca

en su presentación también que el contenido de la ley no estaba cerrado ni era inamovible que estaba dispuesto a escuchar aportaciones

y a incluirlas taldeen proposamenak

a través de varios parlamentarios el gobierno vasco retiró un minuto antes de votar su devolución retiró el proyecto de ley de administración pública vasca hace

muy pocas semanas este grupo grupo parlamentario popular a pesar de concurrir

como ustedes también recordarán no lo hizo el proyecto de ley era torpe era impreciso técnicamente e incoherente estructuralmente

relativo a la seguridad jurídica dicho de otra manera la calidad técnica normativa

ausencia en una ceremonia de la confusión legislativa se mezclaban materias distintas perfectamente delimitadas y por tanto susceptibles de configurar como también

disposiciones diferentes todo ello nos podría haber conducido a la petición de devolución del proyecto esta podía haber sido en aquel entonces en aquel momento nuestra opción pero valorando

intentamos dotar de coherencia al texto clarificar los mensajes y delimitar los contenidos regulatorios y por lo tanto como ustedes también recordarán quisimos entrar al debate de aquel proyecto presentando

enmiendas parciales porque creemos que es bueno porque creemos que es necesario que haya una ley que regule la transparencia

y el buen gobierno en un marco ético para que nuestras administraciones nuestras instituciones recuperen por otro lado la credibilidad o intentemos ayudar a que recuperen la credibilidad

que merece nuestra sociedad cabe recordar

digo de este parlamento que la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno

un gran número de comunidades autónomas también de nuestro entorno han aprobado eso sí con diferente amplitud

leyes de transparencia que también ha servido de referente y modelo hay que confesarlo para

que presentamos de hecho también cabe recordar y me lo van a permitir que ha sido el partido popular el que ha liderado desde el gobierno gobierno de españa y desde comunidades autónomas el impulso y aprobación de la regulación normativa sobre la transparencia

necesaria e inaplazable ante una ley que es imprescindible

que también tiene que cambiar la forma de funcionar de nuestras administraciones modernizarlas y adaptarlas a las nuevas exigencias entre otras a las nuevas exigencias

y fue retirado por el gobierno ya llegaba tarde pero entendíamos que además o a pesar de llegar tarde no debíamos

el conjunto de españa se ha incorporado tarde muy tarde a los estados que tienen ley de transparencia nuestra comunidad autónoma aún más tarde pero tuvimos una oportunidad hace semanas y nosotros entendimos en aquel momento que no debíamos desperdiciarla

de la ley cuya responsabilidad es obviamente en exclusiva del gobierno

estábamos prácticamente abocados a que no haya ley de transparencia en esta legislatura por eso en aras del consenso tan necesario en política hicimos el esfuerzo y hasta si me permiten sacrificio político de no hacer lo que nos pedía

que era solicitar la devolución del texto al gobierno pero no fue posible por eso hoy señorías lamentablemente nos encontramos debatiendo sobre la elaboración de un proyecto

de encontrarnos elaborando o reelaborando una ley a estas alturas

que el proceso de elaboración de un proyecto de ley hasta su presentación en el parlamento tiene un interprocedimental que es inexorable está trazado por ley

camino que exige un anteproyecto y su sometimiento a diversos informes y dictámenes un trámite de información de audiencia pública que en iniciativas como la que se plantean

provocan una amplia participación pública de hecho en el proyecto retirado por el gobierno se pueden contar alegaciones de más de sesenta y cinco entidades

por eso señorías hoy lamentablemente hoy lamentablemente nos encontramos debatiendo sobre el reinicio de un camino que ya se había empezado a andar hoy podemos afirmar sin temor a equivocarnos que según los plazos que les he enumerado y que son

legislatura nuestra comunidad autónoma se quedará también probablemente sin ley de transparencia como dijo un clásico unos por cartas de más

de menos tuvimos una oportunidad para debatir ya para estar debatiendo ya en ponencias sobre todo esto que hay un consenso generalizado

otros con otras el gobierno defendiendo la suya pero podíamos estar ya en la arena debatiendo

de estas características nosotros somos críticos con este retraso creemos que por mucho que se exija al gobierno los plazos van a imposibilitar que podamos aprobar una ley de estas características pero en cualquier caso

la enmienda de transacción que se somete a consideración de este pleno muchas gracias eskerrik asko sémper jauna erantzunen txandara pasatuz maneiro jauna zurea da hitza

sí gracias presidenta no voy a decir demasiadas cosas pero sí que tengo que decir que es todo como un poco desesperante

es como cansino el procedimiento parlamentario es lentísimo a los grupos parlamentarios les cuesta moverse muchísimo

hace todo lo posible para posponer leyes que son absolutamente imprescindibles y lo cierto es que a finales del año dos mil quince veremos si por fin tenemos en este parlamento un proyecto de ley de transparencia algo que no está asegurado a pesar de la enmienda de transacción

cuyo contenido está muy bien y que vamos a votar todos pero es ciertamente cansino que mantengamos este ritmo cansino en relación a asuntos que son muy

pero es falso no todos hemos planteado las mismas cosas las mismas exigencias ni hemos defendido los mismos postulados es falso este mismo debate se produjo ya en el año

muy poco exigente hubiera sido aconsejable que en aquel debate hubiera salido aprobada una transaccional como la que se va a aprobar hoy y seguramente ya a día de hoy tendríamos una ley de transparencia digna de tal nombre pero lo cierto que todo se retrasa y por eso digo que es muy desesperante y muy cansino hay grupos políticos y parlamentarios que llevan el ritmo del caracol es muy cansino es muy cansado nosotros defendimos en noviembre del año dos mil once

pedimos al gobierno de españa en noviembre de dos mil once con cinco únicos diputados en el congreso de los diputados que el gobierno elaborara una ley de transparencia que considerase el derecho a la información como un derecho fundamental y que incluyera una serie de requisitos que son los que yo hoy mismo he defendido aquí y defendí en noviembre de dos mil trece

rechazó esa iniciativa de upyd para elaborar una ley de transparencia la rechazó porque los gobiernos habitualmente no suelen querer

o hacen lo posible para que su contenido sea en fin lo más suave posible y lo cierto es que españa no se ha incorporado a esos países que citaba el señor sémper con una ley de transparencia no se ha incorporado todavía no se ha incorporado tenemos una ley de transparencia nacional muy lejos de los estándares que prevalecen en otros países de nuestro entorno muy lejos el derecho a la información tiene que ser un derecho fundamental en los ciudadanos tienen que saber el destino de cada euro de dinero público y hay mucho trabajo por realizar y lo cierto es que nos encontramos sí en dos mil quince debatiendo sobre un asunto sobre el que debe debatirse señor portavoz orbegozo

en un pleno de control para qué estamos sino los grupos de la oposición únicamente para decir amén y confiar

pero nosotros queríamos asegurarnos que se llevarán a cabo y además hemos firmado o han firmado ustedes una transaccional que viene bien para instar al gobierno y que le pone deberes evidentemente

traiga una ley de transparencia digna de tal nombre cuanto antes es evidente que este gobierno no quiso que se aprobara esa ley de transparencia no quiso por eso lo pospuso todo lo que pudo por eso se negó permanentemente a dialogar con el resto de grupos parlamentarios se negó

podía haber hablado con un servidor que parecía que podía ser el voto decisivo en relación a esa cuestión o con cualquiera de ustedes que son tan importantes como yo en esta cámara

el gobierno vasco y el señor erkoreka y el lehendakari no movieron un dedo para hacer todo lo posible para que esas enmiendas de totalidad se rechazaran y se incorporasen las enmiendas parciales presentadas por el resto de los grupos que resulta que al día siguiente el señor erkoreka sí estaba dispuesto a incluir

pero nosotros evidentemente vamos a hacer todo lo posible y el gobierno vasco demostró una inmensa prepotencia y una en fin grave irresponsabilidad también irresponsabilidad absoluta en fin

los ciudadanos con un solo clic tengan acceso a toda la información disponible para conocer el destino de cada euro de dinero público y que la información

absolutamente eso es lo que nosotros queremos eso es lo que nosotros queremos

y todavía estamos en estas otra vez hablando otra vez de lo mismo en fin yo me quedo con el acuerdo pero también hubo acuerdo en noviembre de dos mil trece y dos años después o año y media después seguimos estando como estamos

es buena su contenido es bueno queremos que se cumpla cuanto antes gracias eskerrik asko maneiro jauna

sí gracias presidenta no tenía yo intención de participar de tomar parte en

sobre todo porque la manera de plantear las cosas

en fin susceptible de entender que hay una disposición al acuerdo pero luego me sorprende enormemente lo que me dice

es decir que esta moción es absolutamente innecesaria porque ya había un compromiso por parte del gobierno

y sin embargo a renglón seguido se pone usted a hablar del contenido de la ley fallida y retirada por el gobierno

en el uso de la palabra tiene el derecho de decir lo que crea oportuno y de hacer la defensa de sus posiciones de la mejor manera

posible decía usted que ya afirmó el señor consejero que iba a tener un contenido estos nuevos proyectos iban a tener un contenido que no iba a estar cerrada ni inamovible hombre bienvenido bienvenido

razón por la que no se pudo entrar a debatir esto primero porque él retiró una iniciativa que estaba presentada

necesidades y planteamientos sin consultarlo con nadie ni antes ni después

o dos proyectos de ley que es a lo que le estamos instando que recojan

hay algo que no me cuadra es decir ustedes están tomando una posición digamos más de acuerdo de intentar consensos

al gobierno que usted sustenta a que haga dos leyes y las traiga a este parlamento con el mayor consenso posible y con las aportaciones de todos los grupos pero usted de antemano ya me dice que no están de acuerdo con dos leyes en fin hay una cosa que sí le agradezco

el grupo parlamentario o el partido que sustenta al gobierno no tiene porqué sustentar nunca la soberbia del gobierno y en este caso

se trata de defender lo que acuerda y cuando se trata de defender lo que acuerda se trata de defender la posición de este parlamento

que será el gobierno sustentado por ustedes pero es el gobierno y ustedes son la representación de la ciudadanía en este parlamento señor sémper

quiero decir si al final lo que usted quiere decir es que si

mucho más cerca de la ley pues no lo sé pero usted en cualquier caso con esas enmiendas parciales podía haber presentado tranquilamente una proposición de ley en este sentido para debatirla en cualquier caso solo le ha faltado he estado a punto de pensar que iba a saltarme usted

una oportunidad y la dejamos escapar quiero decir tenemos la opción en estos momentos de

en nada nos presente un proyecto un proyecto bueno dos proyectos de ley que traigan a esta cámara la oportunidad de debatir

la regulación del sector público incluyendo todas las administraciones de la comunidad todas y una ley de transparencia que permita

administraciones públicas y conseguir el rastro de cada euro que nos gastamos ni más ni menos
es de lo que se trata eskerrik asko gallastegui andrea

benetan kezkatzen nau de verdad que venga aquí y que me vuelva a repetir que por fin el modelo español entra también en euskadi a la ley de la transparencia como

hace quince días con ese sarcasmo que le caracteriza con un afán de intentar ofender a este grupo yo no sé si es que ustedes no se leen las enmiendas a la totalidad o es que no las quieren entender y se lo he explicado a usted también nosotros desde euskal herria bildu hemos propuesto que fueran dos leyes por una cuestión de claridad por una cuestión

yo ciudadano de a pie probablemente no piense que vaya a estar ahí mis derechos y las obligaciones del sector público respecto a la transparencia era una cuestión de practicidad de accesibilidad a la ciudadanía pero ustedes como siempre intentan llevarlo no sé a qué afán de ponerse por encima no acabo de entenderlo

del ámbito foral y local ciertamente vino a esta vino a la comisión porque esta

del grupo eh bildu solicitó la comparecencia del consejero porque el consejero no había mostrado en principio ningún tipo de solicitud oficial para venir a la comisión para explicar esta ley es que insisto es que no se trata de que

alegremente graciosamente se decida que van a ser de ámbito foral y local también que no que se trata de que tenemos que hacer un sector público vasco íntegramente eficiente y nosotros lo tenemos clarísimo ámbito ámbito foral y ámbito local que no vivimos en habitaciones estancas que este país tiene tres niveles y hay que asumir que esos niveles tienen que tener una estructuración que yo entiendo que ustedes sigan anclados en no sé qué limitaciones que ustedes se autoimponen de verdad cómo pueden seguir con eso cuando y respecto al tiempo de presentación de la ley

la primera parte incumplida vamos a darle una pequeña parta de culpa al gobierno y esta ley ponía objetivo principal

como el conjunto de administraciones públicas organismos autónomos entes públicos derecho privado etcétera del que

autonómico foral y local de la comunidad autónoma vasca zer gertatzen zen

que cuando el gobierno hizo su programa legislativo no sabía cuál era su ámbito cuál tenía que ser el ámbito de aplicación de esta ley porque

que la ley de administración pública vasca era para el ámbito autonómico foral y local

de mover fantasmas de que inconstitucionales de que no cumplimos esto de que no cumplimos aquello como hizo el señor erkoreka cuando retiró la ley de manera torticera

creo que es un acuerdo que nos pone en una buena posición

vayamos por ahí y dejémonos de volver a mover no sé qué fantasmas y no sé qué intenciones torticeras que no nos llevan a ningún sitio eskerrik asko pinedo andrea

guk saiatu gara lo que hemos intentado hacer nosotros es exponer

si no hemos intentado explicar que aunque no compartimos muchos planteamientos que se han hecho en esta cámara por los distintos grupos

en función de eso siendo realistas ante nuestra posición en esta cámara pues creemos que

tan necesarias se aprueben entendemos que es conveniente es mejor es necesario es positivo que

sobre estos puntos y los asumimos y los asumimos precisamente por eso porque asumimos nuestra posición

hemos intentado ni engañar a nadie ni emplear métodos torticeros

pasos a dar para plantear una nueva ley de administración pública lo que quería decirle antes al señor maneiro es que hablando de cansinos de ritmo de caracol

esta moción es sobre algo que ya se ha confirmado por el gobierno que lo está haciendo que ya está dando esos pasos

esta es una iniciativa para demandar al gobierno vasco algo que ya se ha comprometido a hacer por partida doble

que si fuera una moción planteada para instar al gobierno a hacer algo a lo que se ha negado

alguna cuestión fundamentalmente a la señora gallastegui

de portavoces quizás también tuvimos una oportunidad

escapar y lo que sucede es que esa

y debatiremos pero fíjense lo diferente que hubiera sido que ante un proyecto de ley criticado por la oposición por los grupos parlamentarios un proyecto de ley que presenta el gobierno eso entra dentro de la lógica del parlamentarismo

se manifiestan se posicionan ahora podríamos estar en un seno

debatiendo sobre todo aquello que estamos poniendo hoy sobre la mesa ya estaríamos debatiendo ya estaríamos elaborando y probablemente el señor maneiro estaría menos cansado y tendría menos pereza aunque solo sea

para aplacar su pereza su cansancio y estaríamos ya debatiendo

y fíjense cuando ahora le pedimos al gobierno espero que

cuando le estamos pidiendo al gobierno que remita un proyecto de ley a esta cámara estaríamos en disposición probablemente de estar aprobando esa ley bueno sea como sea hemos perdido una oportunidad vendrán otras

por favor no somos ni tan buenos tampoco ni tan malos como nos creemos pero nos faltan muchas cosas en este parlamento y en esta comunidad autónoma son herramientas legales legislativas que nos pongan a la vanguardia hay otros que ya lo han hecho nosotros llegamos tarde pero lleguemos porque si no